gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros en su iniciativa el señor isasi habla
y denuncia una supuesta campaña promovida y llevada a la práctica por parte del delegado del gobierno carlos urquijo contra el uso del euskera y la normalización lingüística si existiera tal propósito obviamente habría que censurarlo tanto la supuesta campaña

del delegado del gobierno sin embargo no hay tal campaña y por tanto no hay nada que censurar kanpainarik ez dago kanpaina da isasi

en fin víctima de sus propias obsesiones lingüísticas que le ciegan políticamente y le impiden dar lo mejor de sí mismo y que seguramente le impiden ser

particular campaña sí su particular campaña contra el euskera porque no hay mejor forma de atacar el euskera que utilizarlo de manera sectaria ni siquiera su actitud favorece al euskera al contrario

ha tenido históricamente dos enemigos quienes trataron en su momento de prohibirlo y quienes pretenden ahora imponerlo efectivamente el euskera como se ha dicho vale para cualquier cosa para defender la libertad

obsesiva e impositiva lo importante en todo caso no es el continente sino el contenido inportantea da edukia ez ontzia

a los enemigos del euskera reivindicamos la libertad lingüística y la libre adhesión de la ciudadanía

los inaceptables abusos las medidas coercitiva y la imposición más obtusa

el señor isasi víctima por lo tanto de sí mismo y de sus obsesiones lingüísticas

o acuerdos adoptados por diversas instituciones entre ellas la remisión de actas únicamente en euskera carteles de señalización en

en determinadas instituciones de la bandera española determinados planes de euskera contrarios a derecho

y supondrían un insulto y un desprecio a las víctimas del terrorismo homenajes a miembros de eta excarcelados la inclusión del euskera como una exigencia en las contrataciones públicas carteles a favor de los presos de eta

o la pretensión de udalbiltza de impulsar la creación

vasco en todo caso el señor isasi se centra en aquellas actuaciones del delegado que tienen que ver con la política lingüística o el euskera

las actas únicamente en euskera la explicación en todo caso vale para todos los casos el delegado del gobierno recurre y los tribunales dictaminan y parecer ser por cierto que en un altísimo porcentaje de casos le dan la razón

y la correcta aplicación de su normativa promoviendo o interponiendo conflictos de jurisdicción de atribuciones recursos y demás acciones legalmente procedentes es decir defender la ley y su cumplimiento y esa es por lo tanto la función que cumple ya digo

cuando lo considera procedente y los tribunales dictaminan teniendo en cuenta que bildu

y que gobierna la diputación foral de gipuzkoa es lógico que al señor delegado de gobierno se le acumule el trabajo de hecho quizás necesite en breve ampliar la plantilla nosotros en todo caso respetamos el trabajo que realiza y además de eso

lo que dice nuestra enmienda de totalidad proponemos que el parlamento vasco reivindique y defienda el respeto al estado de derecho y el cumplimiento de la legalidad vigente

inaceptables en una democracia no solo los ciudadanos sino también las instituciones y gobiernos deben respetar estrictamente la ley

declare que todas las lenguas y entre ellas el euskera son vehículos de comunicación entre personas y que censure todas aquellas decisiones y actuaciones

a conciudadanos por razones lingüísticas y proponemos también que este parlamento declare que el euskera ha tenido y tiene básicamente dos enemigos

egun on guztioi voy a empezar recordando algunas cosas que no debería ser necesario repetir

creo que es necesario decirlas lo primero es que la consideración de una lengua como lengua oficial en una comunidad autónoma supone que la relación entre administraciones radicadas en su territorio esa lengua puede ser utilizada efectos legales tener que recordar esto es una muestra de cómo está ahora mismo el cariz que está tomando la situación

es plenamente válido y produce plenos efectos jurídicos sin necesidad de tener que acompañarlo del correspondiente texto en la otra lengua oficial

que en euskadi nos dotamos de una ley la ley básica del euskera que se asentó un amplio consenso en la materia un consenso consistente un consenso que ha sido alabado

como una de sus mayores fortalezas y es en esa ley del euskera en la que se exige que las administraciones públicas utilicen de forma simultánea y conjunta ambas lenguas oficiales en sus actos resoluciones documentos oficiales

entre otros documentos sean publicadas en ambas lenguas y también es importante que recordemos cuáles fueron los documentos de un consenso lingüístico con esas características en primer lugar porque se entendió que dadas las características socio lingüísticas del país

que pensemos en cuáles son las características socio lingüísticas de euskadi cuál es la planta lingüística en la que nos movemos en los dos idiomas

mucho mas extendido y amplio del que correspondería a esa realidad y aunque hay incumplimientos hay que reconocer que así ha sido en la práctica

el uso del euskera en las administraciones públicas es mucho más extenso que la realidad social

y el segundo fundamento de ese consenso fue la necesidad de proteger los derechos lingüísticos de quienes solo conocen una de las lenguas oficiales

la carga de requerir los documentos en la lengua oficial de su

todos sabemos que el ejercicio de ese derecho sigue siendo una carga con implicaciones muy difíciles de llevar en muchos lugares de nuestro país

hay concejales que no saben euskera no reciben las actas en castellano o las comunicaciones de su ayuntamiento y no las reclaman traducidas porque el ambiente les condiciona

por último quiero resaltar que el pacto lingüístico que tenemos ha permitido la promoción del euskera durante treinta y tres años ya sin conflictividad porque hemos respetado el derecho de los ciudadanos a la libre elección de lengua

y la obligación de los poderes públicos de garantizar ese derecho el ayuntamiento es una institución pública y eso ha permitido avanzar en la promoción del euskera que se ha hecho

y dedicando recursos cuantiosos todo eso ha sido posible gracias a respetar las bases de un acuerdo amplio un acuerdo político y social que ha sostenido la aplicación de una buena ley basada en el interés del euskera y en la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos dos aspectos

y que si queremos anular a una la otra se va a caer pensémoslo pues a pesar de esa realidad hace unos días la consejera y el viceconsejero

de las actas municipales en las dos lenguas oficiales con eso el gobierno vasco está pretendiendo eludir el pacto sobre el que se asentó

de modificarlo esto es políticamente inaceptable para quienes como nosotros fuimos parte indispensable de aquel consenso si el gobierno o el pnv quieren romper aquel pacto pretenden modificarlo o pretenden un nuevo pacto que lo hagan expresamente y lo planteen en el parlamento

pero que sea consciente de lo que supone romper aquel pacto

se sienten capaces de imponer el uso exclusivo del euskera con qué fundamento van a exigir

allí donde no hay vasco hablantes o donde su número es insignificante o simplemente minoritario teniendo en cuenta además que no existen municipios

de euskaldunes uno de los municipios en cuestión bergara por ejemplo tiene un sesenta y ocho por ciento de euskaldunes el treinta y dos por ciento

no tiene que leer los avisos en el ayuntamiento en la lengua que conoce de su ayuntamiento de su institución pública es irresponsable

muy graves el gobierno vasco está poniendo el peligro la paz lingüística en la que fundamentalmente

pero si sigue por esta vía el gobierno tendrá que asumir su responsabilidad por haber contribuido a su ruptura y por haber desencadenado un proceso de consecuencias imprevisibles

a la ley del ochenta y dos a la ley del euskera usando el proyecto de ley municipal modificaciones en algún caso de calado como que las actas acuerdos etcétera

siempre que no se lesionen estoy citando textualmente lo que dice el proyecto del gobierno

los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente

ya no tiene derecho lingüístico de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales según esto sino que tiene que alegar que no conoce el euskera para que puedan permitirle o suministrarle en el idioma que conoce

lo enfatizo y lo repito por la importancia que tiene es uno de los pilares del consenso y solo podrá ejercerlo

y cómo hará eso jurando que no sabe euskera cómo lo hará porque eso lo pone el proyecto de ley pero en cualquier caso desaparecería uno de los pilares de la ley del euskera la libertad de elección de la lengua eso está escrito y eso es así pues bien los socialistas no estamos de acuerdo con esa intención porque la ley del euskera

por reunir de forma equilibrada todos los elementos relacionados con el euskera y por basarse en un consenso político

que la hizo posible lo que exige que desde el punto de vista político no se altere si no es de forma expresa y consciente de que se está alterando lo estipulado en ella con la transacción que han alcanzado hoy el pnv y bildu

e insisten en un enfrentamiento artificial y sobre todo perjudicial

la forma en que han alcanzado esa transacción con todo el respeto

indica la fractura que se está produciendo hoy aquí porque habitualmente en mi caso yo trato con todos los grupos cuando alguien tiene una iniciativa se dirige a mí el señor isasi con el que mantengo una buena relación lo hace habitualmente y en este caso

yo sé que no es por desprecio es porque considera que debe de tomar un camino en el cual solo puede acompañarle el pnv

de esa transacción siquiera del intento de acoger en

a los socialistas es decir la comunidad nacionalista de forma consciente está hoy aquí introduciendo

pero el hecho es lo que estoy contando para terminar les diré que los socialistas queremos huir de las posiciones rígidas que llevan el conflicto en sus propias entrañas como lo que estamos viendo hoy aquí queremos una relaciones internas en euskadi entre sus administraciones

el carácter simultáneamente oficial de ambas lenguas pero garantizando al mismo tiempo en la relación con los ciudadanos y entre ellos hay que destacar a los concejales que estos no tengan que soportar ninguna carga por exigir los documentos en la lengua que conocen especialmente cuando

ello supone marcarlos públicamente por eso mantenemos nuestra enmienda que pretende que este parlamento reafirme la validez del pacto lingüístico para garantizar todos los derechos lingüísticos de la ciudadanía y también al mismo tiempo y al mismo nivel la protección del euskera gracias

ofizialtasun betea batzordean entzun genuen bezala la validez de ambas lenguas es un principio constitucional y estatutario

el señor urquijo en bastión de los intereses de españa

muchas gracias señora presidenta señorías los nacionalistas no es la primera vez que lo décimos en esta cámara

han tratado siempre de patrimonializarlo además de una manera

han manoseado conceptos que todos hemos compartido durante muchísimos años

que sirva para unir siempre han tratado de utilizarlo para dividir

la voluntad y el esfuerzo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca que ha estado que está con el euskera que ha hecho un esfuerzo compartido por recuperar la lengua pero que mayoritariamente defendió la convivencia lingüística que mayoritariamente esta sociedad

una comunidad bilingüe construir un país bilingüe que sepa respetar que sepa compartir el partido popular como la mayoría de la sociedad vasca ha defendido

el uso del euskera y el castellano como lenguas propias de nuestra comunidad con naturalidad sin imposiciones reconociendo nuestra realidad sociolingüística

las diferentes realidades sociolingüísticas de nuestra comunidad la promoción del euskera el respaldo social el esfuerzo de la educación

en la tarea de la euskaldunización la ilusión a lo largo de estos treinta y cinco años el también

que quisieron hacer un esfuerzo para no perder oportunidades el esfuerzo y el sufrimiento de tantos yo soy diputado por álava qué esfuerzo ha hecho la sociedad alavesa

durante estos treinta y cinco años esfuerzos a la altura de los guipuzcoanos que ya conocían la lengua cuántos bilbaínos cuántos alaveses

a cuántos vascos se les ha cerrado las puertas de la administración cuántos vascos han perdido oportunidades de trabajo pero han asumido que tenían que realizar un esfuerzo cuánto sufrimiento ha habido también en la educación cuántos profesores han sido desplazados porque había que

porque esta sociedad estaba comprometida por hacer de nuestra comunidad una comunidad bilingüe

cuánto esfuerzo quieren ustedes con su fundamentalismo lingüístico tirar por la borda

enemigos del euskera se lo decían antes son estos nuevos talibanes de la lengua los nuevos talibanes de la lengua el nacionalismo radical de bildu que se pasa los consensos por el arco del triunfo que buscan la confrontación permanente y que pone al euskera siempre en la picota no son

estos debates en esta legislatura son ustedes siempre son ustedes los que traen este debate y ponen al euskera en la picota al servicio siempre de su estrategia política

y el nacionalismo gobernante ese que deja hacer como siempre hizo durante estos treinta y cinco años en este ámbito y en otros el nacionalismo gobernante que deja hacer

en esa equidistancia entre el cumplimiento de la ley y el incumplimiento de la ley difícil equidistancia desde hace algún tiempo señorías

perfectamente diseñada desde bildu y su entorno

terminar con el bilingüismo porque no les gusta

bilingüe una estrategia perfectamente diseñada para incumplir la ley para testar

es una estrategia perfectamente diseñada desde los ayuntamientos

para testar mediante la provocación y mediante el incumplimiento de la ley para testar la respuesta de las instituciones están testando la respuesta de las instituciones están testando la respuesta del gobierno central y del gobierno vasco a sus provocaciones están testando la respuesta para conocer exactamente si pueden hacer lo que les da la gana o no y hasta qué punto van a recibir la respuesta

que ponga al euskera en el foco de la confrontación política buscan ellos siempre antes de cada elección y estamos por delante de unas elecciones municipales buscan siempre un escenario de confrontación que ponga al euskera

en el foco del debate político y además buscando enemigos fuera en este caso volviendo a buscar enemigos fuera tratando de engañar a la sociedad señor isasi

y escondiendo las vergüenzas de un nacionalismo que controla todo el poder en el país vasco que es un hegemónico en gipuzkoa un nacionalismo que es hegemónico en gipuzkoa y que trata ahora

trata de esconder que es incapaz hacer avanzar el euskera en gipuzkoa sí ustedes ustedes que gobiernan gipuzkoan que mantienen un poder hegemónico en gipuzkoa con el paraguas del partido nacionalista vasco en las instituciones vascas ustedes que controlan las instituciones forales y municipales guipuzcoanas incapaces de reconocer que sus políticas de imposición no hacen avanzar el euskera sino todo lo contrario pero tratan de ocultar eso tratan de ocultar que esas políticas que con sus políticas no se avanza y tratan de echarle la culpa al delegado del gobierno sí y

porque trata de que algunos ayuntamientos cumplan la ley en defensa de los derechos de algunos ciudadanos

y que lo único que hace ese delegado del gobierno es defender la ley las leyes vascas las leyes aprobadas por este parlamento las leyes aprobadas por este parlamento sí la ley del uso del euskera sino otras leyes por supuesto que ustedes están buscando incumplir otras leyes la constitución pero ustedes están también incumpliendo desde sus ayuntamientos las leyes que promulgó este parlamento por mayoría absoluta ustedes desde luego demuestran que las leyes de este parlamento pues les importan un bledo solo les importan cuando favorecen

y sus estrategias políticas y es preciso denunciar a nuestro juicio una campaña impresentable además de injusta contra el delegado del gobierno

todo nuestro apoyo y que queremos darle desde aquí todo nuestro apoyo para que siga haciendo lo que está haciendo

claro tiene que recibir desde aquí no solo nuestro apoyo sino además escuchar nuestra denuncia contra esta campaña injusta e impresentable contra su labor porque

hay que tener mucha valentía para enfrentarse con ustedes con todos sus focos mediáticos sí

y además les vamos a explicar de qué recursos estamos hablando porque quiero que se enteren la mayoría de la cámara de qué recursos estamos hablando a día de hoy no hay novecientos recursos

no se han interpuesto sesenta y ocho recursos motivaciones de distinta naturaleza básicamente tres

del conocimiento obligatorio del euskera en los pliegos de contratación de las administraciones no estamos hablando

en que si se comunican sí también pero no estamos hablando de comunicaciones entre administraciones estamos hablando la exigencia del conocimiento obligatorio en la relación con las administraciones

en una decisión del delegado del gobierno sino en un expediente de investigación abierto por la unión europea al reino de españa como consecuencia de una

un eurodiputado de otro grupo en este caso de upyd por discriminación lingüística fue la unión europea la que impulsó esa denuncia de esos treinta

de la delegación del gobierno por el tribunal superior de justicia del país vasco que no nos tenemos que ir a murcia que ha sido el tribunal superior de justicia del país vasco el que ha resuelto a favor del delegado del gobierno en relación con el recurso

dirigidos por ustedes se han achantado han reculado

solo quedan vivos seis pero es que les voy a decir a qué se deben los recursos dos apartados en la concesión de ayudas que dice que la memoria justificativa de la subvención

que dice que se redactará en euskera para pedir una subvención en ese ayuntamiento

el tanto por ciento de la subvención se dice que se obtendrá de la siguiente manera uso exclusivo del castellano cero por ciento de subvención en el caso de uso exclusivo del euskera para la difusión de la actividad cien por ciento de la subvención oiga pero esto no obstante ustedes están de choteo o qué se están ustedes cachondeando de esta sociedad de este país de los ciudadanos de los ciudadanos que viven en zarautz y que no conocen el euskera esta es su manera

de los que no saben euskera en su municipio ustedes dicen que aquí hay una campaña del delegado del gobierno esto es una vergüenza

ustedes están haciendo en los ayuntamientos de la vergüenza

que soportar de lo que harían ustedes si llegasen si tuviesen más

señor isasi pero si son ustedes los que vulneran los derechos de la gente están obsesionados cansan aburren a las ovejas

las personas no son utensilios a su servicio las personas están por encima de las lenguas las personas no pueden ser utilizadas para imponer una lengua u otra

el objetivo final es defender los derechos de los ciudadanos no los derechos de las lenguas las lenguas no tienen derechos estamos siempre con lo mismo diciendo cosas básicas que lo entiende cualquiera

porque están obsesionados porque anteponen una determinada lengua a los derechos de los ciudadanos que ustedes han venido pisoteando durante largos años esa es la realidad y hemos estado callados y en silencio demasiado tiempo

o por buenos determinados planteamientos que ustedes han realizado en lugar de decir que no que no tenían razón

inmensos abusos en euskadi como consecuencia de las políticas lingüísticas que se han aplicado esa es la realidad hemos estado demasiado callados incluso cuando gobernó el partido socialista que en lugar de modificar determinadas leyes y corregir determinadas actuaciones prácticamente no modificó nada demasiado tiempo

de miles de personas que han tenido que soportar una política lingüística abusiva miles de personas que han tenido que irse incluso de euskadi porque no encontraban aquí trabajo en la administración pública ustedes eso todo lo olvidan les importa un bledo

la obsesión la lengua el euskera para ustedes es más importante el euskera que cualquier persona claro es que ustedes son nacionalistas ese es el problema las actas deben ser publicadas en ambas lenguas sí

pero es que no estamos únicamente hablando de la ley porque vulnerar la ley

es que incluso lo grave es que con esta iniciativa y con las intervenciones suyas señor isasi y con la intervención de la portavoz del partido nacionalista vasco lo que en última instancia pretenden hacer es anteponer una lengua a las personas y no vamos a admitirlo nunca

víctimas de sus obsesiones pretenden fracturar la convivencia levantar muros entre conciudadanos incomunicar

qué contradicción defender una determinada política lingüística

y obstaculizan evidentemente impiden tratan de perjudicar el trabajo político de decenas de concejales porque quieren en última instancia censurarlos

eso es lo que pretenden hacer las lenguas señor isasi son para comunicarse no son para otra cosa todas lo absurdo por lo tanto es utilizarlas

o para obstaculizar la comunicación entre personas usted ama el castellano

ni amo el euskera yo amo a las personas

los derechos de los ciudadanos yo no amo el euskera no amo el castellano es un vehículo de comunicación es un instrumento para que las personas puedan comunicarse entre sí este es el objetivo fundamental señor isasi no lo entiende tienen remedio los nacionalistas pues difícilmente tienen remedio los nacionalistas por que ya digo

que las lenguas son para las personas no para las lenguas las lenguas son para las personas si no hubiera personas no habría lenguas no admiten esto no tienen remedio ustedes me temo no tienen remedio las personas no somos objetos

qué es lo que hará el señor carlos urquijo conociéndole es posible pensar que vaya a continuar en su línea pero en todo caso upyd tampoco se va a callar

cosas que ustedes dicen que no pretenden más que vulnerar y pisotear los derechos de la ciudadanía

miguel de unamuno el nacionalismo es la chifladura de exaltados echados a perder por indigestiones de mala historia

nosotros vamos a seguir defendiendo la convivencia y la libertad

berriro señora mendizabal acaba de decir usted que el euskera está por encima de los partidos eso es una obviedad que comparto pero de eso que dice sacará una consecuencia

que todos los partidos que habrá que buscar que todos los partidos trabajen a favor del euskera por el euskera y cómo se casa eso con que la comunidad nacionalista hoy aquí haya buscado una transacción en exclusividad sin buscar otros acercamientos

un consenso que ha sostenido el impresionante avance del euskera

hoy aquí isasi jauna laguna dice usted

en esta institución donde hay traducción simultánea constantemente donde se traducen los textos escritos y aún así si alguna vez por algún fallo o una falta de recurso no hay no existe

creo de verdad que es una distorsión de la realidad tan fuerte basada en algo que es tremendo para lo que discutimos hoy

fundamentalmente voluntarista respecto a la política lingüística y ahí está gran parte de la sustancia del desaguisado que están cometiendo hoy el pnv y bildu al unísono el voluntarismo por encima del consenso

por encima de la realidad y la adecuación a la realidad mirando al futuro y al progreso de la lengua ahí está fíjese hace unos días en la comisión

dijo usted que la constitución española no apoyaba el euskera y yo le conteste claro que usted estaba pensando de forma voluntarista hasta el punto de que se olvidaba de que el estatuto creo que piensa que algo ayuda al euskera no es constitución española

la constitución española es la garantía incluyendo el estatuto que nos hemos dado y que de mutuo acuerdo aquí en casa dentro en este país que hemos decidido cómo tenía que sostenerse

está el apoyo de todo lo que estamos hablando hoy de todo lo que se ha desarrollado el euskera ahí no en movimientos que tienen importancia

en una coyuntura política tratan de o romper francamente ese consenso o

ese consenso ahí está la fuerza del euskera en el consenso

niega la realidad porque se queja de algún fallo cuando el tratamiento del euskera en las instituciones en aquellas que cumplen esa ley que nos hemos dado es

muy por encima de la realidad social de la planta lingüística de este país porque si se aplicaran las políticas lingüísticas en función del desarrollo de ambas lenguas sería impensable

en promoción lingüística en promoción del uso en obligar legalmente como hemos obligado todos por consenso

atiendan el derecho de los ciudadanos de la libertad de elección de lengua

y nosotros no solo compartimos eso es que si no hubiera sido por los socialistas en el ochenta y dos eso no hubiera avanzado

hasta aquí no hubiera sido eso así por los socialistas no hubiéramos llegado a donde estábamos y eso es evidente y no es que queramos que lo reconozca la comunidad nacionalista

el consenso en el cual se basa todo el avance que hemos tenido le parece a usted señor isasi y a la señora mendizabal al pnv que hay que respetar los derechos de los ciudadanos

sí o no es muy sencillo porque si dicen que sí deben de retirar la transacción a la que han llegado hoy y si dicen que no mostrarán que tienen una actitud fundamentalista respecto a la lengua basada en el voluntarismo que nace de más allá de lo que los derechos ciudadanos y la convivencia pueden permitir y ahí
no nos van a encontrar eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea en la comisión celebrada el lunes se dio por el gobierno

bastantes argumentos de peso por los que queda totalmente clara la legalidad de la actuación municipal al redactar las actas en euskera la publicidad

idiomas no implica en absoluto la obligación de redactar las actas en ambas lenguas tal y como se explicó a día de hoy ya hay resoluciones judiciales contradictorias al respecto por lo que no se puede decir que esas actuaciones municipales son ilegales la interpretación que hace de la ley del euskera este parlamento es contraria a la que hace el delegado del gobierno de españa en cualquier caso este parlamento

cualquier duda interpretativa que como torticeramente hace el delegado del gobierno de españa pues eso

se evitará por la vía legislativa con la ley municipal

señor oyarzabal cuando dice que los nacionalistas instrumentalizan el euskera si usted a la palabra nacionalistas añade españoles estaremos totalmente de acuerdo con lo dicho y en este mismo sentido

que hay intereses en romper el consenso que logramos con la ley del euskera señor reyes usted sabe que es mentira lo que ha dicho sobre

que no se ha planteado un consenso esta misma mañana le he hecho yo un planteamiento de negociación que ha rechazado porque posiblemente estaba usted más cómodo con un discurso más equidistante

que el único que no puede entrar en la administración es el que no sabe castellano artículo tres de la constitución hogeita hamasei urte pasa dira

sí estamos de acuerdo en que hay que respetar los derechos de los ciudadanos pregunta contestada

obligaciones obligaciones para dar respuesta a los derechos del resto de los ciudadanos

y por poner un ejemplo hasta puede acercarse a la lengua vasca pero que deje a los ayuntamientos de euskadi trabajar y realizar las tareas correspondientes

mire creo que es muy importante saber de qué estamos hablando entonces les voy a leer una sentencia

porque en relación con el ayuntamiento de zarautz

un apartado del pliego en la concesión de subvenciones del ayuntamiento de zarautz dice en la concesión

se procurará utilizar el euskera en caso de utilizar las dos lenguas oficiales se priorizará el euskera anteponiéndolo al castellano y repitiéndolo al menos dos veces más apartado quinientos la memoria justificativa de la subvención se redactará en euskera o

pero el tanto por ciento de la subvención obtenida producto de la aplicación baremación de los criterios anteriormente detallados será el detallado a continuación pliego de condiciones

en el caso de que haya un uso bilingüe en la difusión de la actividad como máximo

de la subvención si hay un uso bilingüe de la difusión y además de la realización de la actividad como máximo

ahora si el uso es exclusivo del euskera en todas las actividades de la difusión y la actividad

es la broma de la que les hablaba antes no puede admitirse según el tribunal vasco

esa redacción exclusivamente en euskera para en la relación con la administración tampoco en la relación

porque efectivamente se plantea una relación no solo

actividades que vayan a realizarse en euskera sino que también se vulnera la regla

en el derecho de los castellanos a conocer la programación municipal y asistir a actividades programadas por el ayuntamiento porque desde luego el ayuntamiento no realiza

la actividad de fomento de la cultura no puede restringirse solamente a una de las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma sin excluir indebidamente de la asistencia a las actividades subvencionadas a todos los vecinos que incluyan a los que solo conocen

eso significa en el caso de la subvención que hablábamos antes dice el tribunal

pues comporta la exclusión de las asociaciones culturales o sociales que utilicen exclusivamente el castellano

hay ayuntamientos que cuando remiten las actas efectivamente como se ha dicho aquí lo hacen únicamente en euskera incumpliendo el artículo ocho punto dos de la ley de normalización del euskera y lo dice

oiga que dicen que incumple la ley y dice la ley

que ustedes igual quieren cambiar oiga pero cámbienla pero no permitan que se incumpla la ley vengan aquí y cambien las leyes

o resolución oficial que emane de los poderes públicos sitos en la comunidad del país vasco deberán estar redactadas en forma bilingüe a efectos de publicidad oficial y dice todo acto en lo que intervengan los poderes públicos sitos en la comunidad autónoma del país vasco así como las notificaciones y comunicaciones administrativas deberán ir redactados

salvo en que los interesados privados elijan expresamente la utilización de unade las lenguas oficiales de la comunidad que no es el caso bien de estos

hay dos sentencias que dan la razón al delegado del gobierno veinticinco recursos quedan vivos porque en el caso del ayuntamiento de se ha comprometido ya a remitir las actas en bilingüe hay ochos recursos más

también en ocho ayuntamientos dirigidos por bildu la exigencia del euskera a la hora de recibir subvenciones tres se han resuelto a favor

los ayuntamientos han reculado es decir y se ha dicho

la voluntad de llegar a acuerdos hay casi tantos requerimientos previos como

acordada pero los señores de bildu están en campaña y los del pnv les hacen el juego están en campaña porque buscan utilizar otra vez de nuevo el euskera como un instrumento

que nos tengamos que arrojar a la cabeza unos y otros el otro día leíamos que el viceconsejero y eso me parece más grave el viceconsejero bastarrica le leíamos estos días decía que la responsabilidad de los poderes públicos es actuar con prudencia

quiere decir mirar para otro lado cuando incumplen las leyes entonces eso es lo que tiene que hacer según bastarrica pues lo que tenemos que hacer es mirar para otro lado dejar que los señores de bildu

donde tenemos que defender el cumplimiento de las leyes que además emanan de este parlamento vasco

que la primera responsabilidad de los poderes públicos también en la comunidad autónoma del país vasco es cumplir y hacer cumplir las leyes desde luego termino ya señora presidenta creo que el nacionalismo ha demostrado ser experto en tratar de

por encima del cumplimiento de la ley yo por el hecho de pensar en castellano y desenvolverme en castellano no pierdo mi condición de vasco mi abuelo nació en oyarzun mi abuela en azpeitia mi otro abuelo en llodio mi otra abuela en aramaio yo vivo en vitoria

en castellano como la mayoría de la sociedad vasca como la inmensa mayoría de la sociedad vasca
de los que votan al partido popular de los que votan al partido socialista de los que votan al partido nacionalista vasco eskerrik asko señor oyarzabal y me arriesgo a decir

la inmensa mayoría de la sociedad vasca hoy piensa y se desenvuelve en castellano no perdemos por ello nuestra condición de vascos y no estamos dispuestos a renunciar
a uno solo de nuestros derechos eskerrik asko señor oyarzabal simplemente porque ustedes estén dispuestos a imponernos sus planteamientos de manera

bueno como ustedes ya saben la justicia juvenil existe para aportar una respuesta especifica especializada y matizada a las infracciones de menores

existe un amplísimo consenso isiltasuna mesedez en que esta justicia debe tener objetivos propios

y un enfoque multidisciplinar durante todas las fases de la intervención que respete sobre todo los derechos de los menores la ley reguladora que es la ley orgánica cinco barra dos mil de doce de enero como digo la responsabilidad penal de los menores articula el régimen jurídico aplicable a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que infracciones contempladas como delitos o faltas en el código penal y en el resto de leyes penales especiales y como saben también ustedes

sancionar sus conductas y para el cumplimiento de las medidas que les impongan se aplican

el enjuiciamiento corresponde a juzgados diferenciados y el cumplimiento de las sanciones se atribuye a las comunidades autónomas que deberán disponer y deben disponer de recursos suficientes para estos distintos tipos

dotados de las condiciones materiales y medios profesionales necesarios para la función que deben cumplir garantizando en todo momento como digo los derechos de los menores en euskadi el departamento de justicia y administración a través de la dirección de justicia

estas competencias en materia de justicia juvenil como por ejemplo la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de esta ley de responsabilidad penal del menor la organización dirección y gestión de centros

para la ejecución de estas medidas judiciales la creación dirección y coordinación además de la supervisión de los programas en relación con menores y jóvenes

incluso la propia gestión para la ejecución de las medidas judiciales la elaboración de informes propuestas y comparecencias ante el ministerio fiscal y otras series de órganos judiciales en relación con esa situación incluso la situación personal de los menores misión del departamento asegurar la disponibilidad

la ejecución de esas medidas impuestas por los juzgados de menores atendiendo como digo al carácter primordial de la intervención educativa a la búsqueda de la reinserción ejecutiva y asegurando el interés superior del menor como digo en euskadi como decía el sistema de justicia juvenil está

no es la joya de la corona pero funciona razonablemente bien aunque como todo en esta vida es susceptible de mejora es mejorable me estoy refiriendo en este caso a los menores infractores y su tratamiento y a la mejora de los proyectos educativos en orden

planes de intervención específicos dirigidos a estos infractores que aborden de manera multidisciplinar y con mayor efectividad

pero con independencia señorías de que la relación de causalidad

debe provocar una modificación positiva en la actitud de los menores infractores y por tanto en las condiciones de trabajo de los equipos educativos

más terrenal más a pie de pista trata sustancialmente de que el gobierno vasco ejecute

medidas de mejora de esas condiciones de trabajo porque lo que efectivamente no ha sido objeto de actualización y me estoy refiriendo a una actualización en profundidad a una actualización necesaria

pero no es suficiente porque si no no pasaría las cosas que pasan

es el tratamiento y cumplimiento de aquellas recomendaciones recogidas en la propia evaluación del sistema de riesgos

que se elaboró en dos mil nueve de eso precisamente es

en esta iniciativa de hoy se trata señorías de garantizar la seguridad de los trabajadores del centro se trata de garantizar la formación continua de los trabajadores del centro se trata de garantizar muy importante la supervisión psicológica de los trabajadores del centro los proyectos educativos de este tipo los proyectos educativos en centros de intervención

que acoge a menores que han cometido los delitos más graves dentro del amplio abanico la ejecución de estos proyectos ejecutivos requiere de un alto nivel de especialización que se traduce en un trabajo complicado muy complicado queremos por tanto que se empodere a los educadores queremos que se empodere a los equipos que trabajan en el centro con situaciones de tensión muy elevada y que se reconozca el trabajo

que las situaciones de estrés provenientes de situaciones de tensión en el propio centro sean calificados como enfermedad

y no como enfermedad común el gobierno vasco ha asegurado que trabaja con la dirección del centro de menores de ibaiondo y sabemos que es cierto

porque quiere poner en marcha todas aquellas medidas que permitan que el personal pueda desempeñar su trabajo con plenas garantías de seguridad

lo que dice que hace por eso hemos firmado

que yo creo que va a contar con el apoyo de todos los grupos y a los que agradezco de antemano su disponibilidad y sobre todo su actitud colaborativa para mejorar la proposición inicial

y sobre todo muy claramente tan claramente incluso que sería evitable cualquier tipo de intervención para explicar la transacción a la que hemos llegado dice el primer punto es una declaración de principios en la que se insta

al gobierno vasco a mantener una política de justicia juvenil

a través de un proyecto educativo que les posibilite expectativas reales de futuro va de suyo

y además con una trayectoria importante como digo y luego le pone deberes porque entre otras cosas para eso están las proposiciones de ley

y en ese sentido se insta al gobierno para que en el plazo de un mes empiece a ejecutar aquellas recomendaciones recogidas

laborales en colaboración con la dirección del centro y los profesionales muy importante que están relacionados con la protección física de las personas trabajadoras

también a que elabore un protocolo integral de actuación para evitar situaciones de violencia desde el punto de vista educativo sanitario y jurídico aquello que hablábamos

y garantizar las medidas de seguridad necesarias en el centro educativo ibaiondo y en el resto de los centros de justicia juvenil promover la formación continua del personal

psicosociales muy importante esto también es un avance importante que están solicitando desde hace mucho tiempo los y las trabajadoras

que ponga en marcha las medidas necesarias en definitiva para establecer con carácter obligatorio

externa psicosocial de los equipos y responsables educativos profesionales del centro como digo señorías hay veces que da gusto firmar transaccionales fundamentalmente porque creo que el acuerdo ha mejorado sustancialmente la

se presentaron y les agradezco de nuevo su colaboración su actitud para el acuerdo y espero que efectivamente esta

para decir que efectivamente el grupo popular apoyará la enmienda de transacción

y firmada por el grupo proponente nacionalistas vascos y eh bildu retiramos por tanto

porque efectivamente coincidimos en el planteamiento en los objetivos en el fondo de la cuestión planteada por el grupo socialista estamos convencidos de la necesidad de

juvenil dirigida a la reeducación de las personas menores infractoras en las mejores condiciones a través de proyectos

como se dice en esa enmienda de transacción que posibiliten de la mejor manera expectativas reales

para esos jóvenes y que efectivamente además se establezca un plazo para que

recogidas en la valoración de riesgos actualice las medidas necesarias y efectivamente

a partir de ahí se garanticen las medidas de seguridad que reclaman los profesionales estamos preocupados y no queremos solidarizar también

en los últimos meses y esperamos que el gobierno tome las medidas cuanto antes yo creo que se trata aquí de hacerlo cuanto antes mejor

adecuar y asumir los protocolos necesarios en materia de seguridad en los centro de reeducación

primer lugar la enmienda transaccional se recoge un párrafo de nuestra enmienda de totalidad con la que se quiere poner en valor aunque como decía

queremos poner en valor la labor realizada hasta ahora en materia de política y justicia juvenil

y en caso de que estas se produzcan favorecer su reeducación y reinserción social a través de un proyecto educativo que les posibilite expectativas reales de futuro y que hasta la fecha tal como nos explicó hace casi un año el señor consejero de administración pública y justicia el señor erkoreka

respecto a la disminución de las medidas a ejecutar que han disminuido como al fortalecimiento de los procesos de mediación conciliación y reparación como solución a los conflictos con menores de edad así como a la disminución progresiva de un índice importante que es el de reincidencia

a estar a la finalización del tercer plan por debajo del veinte por ciento lo que entendemos que sitúa a euskadi en la vanguardia del estado en materia de reinserción y resocialización

y que contase con el apoyo también de esta cámara por supuesto como decía la señora gallastegui susceptible de mejoras y en eso se está trabajando

hacen referencia a la ejecución de las medidas recogidas en la valoración de riesgos laborales y la elaboración de un protocolo integral de actuación para evitar las situaciones de violencia desde un punto de vista educativo sanitario y jurídico en este sentido en primer lugar hay que poner de manifiesto que estamos hablando del único centro de nivel uno de nuestra comunidad autónoma

en febrero de dos mil uno y en este centro único centro catalogado de nivel uno en nuestra comunidad

y de mayor duración y que atienden precisamente a los jóvenes que presentan una mayor conflictividad lo cual evidentemente conlleva una serie de riesgos laborales inherentes al puesto y a la situación que lógicamente también su reflejo

y que creo que compartimos todos que el objetivo de todos y todas debe ser el intentar eliminar o reducir a la mínima expresión la posibilidad de dichos riesgos laborales señora gallastegui a pesar de prever todos los supuestos es imposible evitar todos los riesgos eso lo compartirá conmigo también aquí en este punto nos gustaría

en este centro y en los centros juveniles de la red entendemos que el internamiento en un centro educativo ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicado tanto para profesionales como para los menores

no obstante también compartirán conmigo que de los datos facilitados por el departamento de justicia a la pregunta formulada por la señora gallastegui se puede concluir que en el centro ibaiondo no hay una situación que pudiéramos considerar de inseguridad

y el correspondiente protocolo de riesgos laborales mejorando todas las medidas de seguridad adaptándose a los nuevos perfiles de usuarios atendidos en el centro

que la transaccional es bastante más completa y atiende mejor a la problemática que se da en este supuesto

los representantes del grupo socialista y eh bildu del informe de riesgos laborales de dos mil nueve y tenemos que manifestar y poner de manifiesto que en el mes de octubre de este año pasado dos mil catorce se ha realizado

en ibaiondo con su correspondiente protocolo es decir

de la misma evaluación y también hay que mencionar que esta evaluación es continua de hecho tanto el comité de empresa

están continuamente detrás de este tema respecto al plazo que se recoge en la enmienda transaccional para ejecutar las recomendaciones la verdad no tiene

se viene realizando ya con lo cual está bien pero ya se está realizando por otro lado es evidente que el perfil de los usuarios atendidos en este centro y en los centros juveniles ha cambiado

de la evaluación del tercer plan de justicia con la aparición de nuevas problemáticas que no voy a hacer referencia ahora y esto debe ser tenido

hace que sea necesario garantizar las medidas de seguridad promover la formación continua y tener en cuenta de manera especial los riesgos psicosociales tal y como se recoge en la enmienda transaccional

en los últimos meses en septiembre de dos mil catorce se firmó un convenio con la institución privada aita menni

hasta esa fecha el tratamiento ordinario se prestaba por osakidetza por tanto vemos aquí una adaptación a esos nuevos perfiles

se ha incrementado el personal de seguridad del centro actualmente en ibaiondo hay dos personas más de seguridad azaldu dudan bezala

hortaz ezin daiteke esan ibaiondoren kudeaketaren aspektu hau alde batera utzi denik fruto de esa dinámica continua a la que me refería ya se ha producido una modificación

para cumplir un requerimiento de la inspección de trabajo respecto a la necesidad de que las salidas del centro educativo se realicen con dos personas de acompañamiento de la persona menor que sale del centro

para estudiar y acordar el establecimiento de las medidas que resulten necesarias

y la próxima reunión será este mes de marzo además se va a facilitar al personal tal y como se recoge en la transaccional y tal y como se venía haciendo se va a facilitar al personal formación específica en materia de autoprotección y también en materia de inteligencia emocional mediante la repetición de un curso que ya se realizó en dos mil catorce zentroan

zaio por lo tanto se están poniendo en marcha todas aquellas medidas que permitan que el personal pueda desempeñar su trabajo con las plenas garantías de seguridad vemos que son hechos y no palabras los buenos resultados a los que hacía referencia al principio de mi intervención se deben

con su problemática lógicamente de la situación en la que trabajan y a las políticas implementadas por el gobierno vasco besterik ez

manifestaciones del representante del grupo nacionalista

bienvenido sea pero lo cierto es que ha habido alguna serie de déficits porque de hecho los trabajadores

participen de manera activa que haya una relación bidireccional entre el departamento y los propios trabajadores del centro y la propia organización del centro para el establecimiento de las medidas

situaciones psiquiátricas y urgencias bien no es eso de lo que se trata cuando estamos hablando de prevención en el sentido de

exactamente igual que el que podemos tener nosotros parlamentarios anualmente con revisiones de tipo oftalmológico de medicina general ginecológico en fin se trata precisamente de eso en situaciones de riesgo psicosocial establecer

de la cuestión en referencia al tratamiento del riesgo

norbaitek hitza hartu nahi du zorrilla jauna zurea da hitza sí simplemente para decir que el convenio

y que también en un momento dado podría ser extensible a los trabajadores y trabajadoras pero creo que es un paso importante de adaptación a esos nuevos perfiles y

asumiendo el departamento respecto al sistema de vigilancia de la salud que es el punto

también ya se exigen de hecho el departamento exige este es el único centro que tiene gestión directa

de justicia juvenil se prestar por gestión indirecta y en esos centros en los pliegos

se exige que haya una supervisión psicosocial y por lo tanto nos parece adecuado que también en este centro se establezca por nuestra parte nada más besterik ez

siempre he pensado que las cosas que salen con un consenso amplio tienen

en euskadi especialmente porque hay muchas sensibilidades políticas y por tanto

no solo hace que ese proyecto sea más duradero sino que también es un proyecto mejor con más puntos de vista y más contrastado esto es exactamente lo que sucedió

en aquel momento la consejera de medio ambiente era la señora unzalu

muchísimas voces muchísimos posicionamientos para conseguir un objetivo común compartido un objetivo especialmente querido y respaldado en la ciudad de vitoria

más adecuada para los montes de vitoria en su figura de protección era la de parque natural por qué digo esto lo digo porque en aquel momento supongo que el partido socialista tuvo su debate finalmente también

la señora unzalu representando al gobierno adoptó esa posición de iniciar el porn una herramienta imprescindible para poder llevar a cabo esta decisión por tanto la suma del partido socialista estaba en este asunto

de esta figura de protección de los montes de vitoria como parque natural estaba el grupo popular que lo ha defendido siempre lo he hecho yo además como alcalde de la ciudad y lo ha hecho además el pleno del ayuntamiento de vitoria en numerosas ocasiones y aquí viene la sorpresa también estaba el pnv

y le miro al señor xabier aguirre que está serio hoy no me extraña porque

lo que decía y lo que pedía a gritos era exigencias al gobierno del señor lópez y a la consejera

de que la única forma de proteger adecuadamente los montes de vitoria era la declaración de parque natural

eso era lo que decía el pnv el mismo xabier aguirre el mismo diputado general es el que después

precisamente por pedir algo así ahora ya eso no vale y ahora el partido nacionalista vasco se ha quedado solo y hay que buscar cuál es la razón por la que se ha quedado solo hay muchas lecturas que se pueden hacer de eso normalmente hay gobiernos donde no todos los consejeros o consejeras tienen el mismo peso y en función de la confianza que tienen

en función del área en muchas ocasiones no solo en esta ocasión desgraciadamente los intereses de las empresas

que medio ambiente y hoy también lo vamos a ver aquí esto sucede

la consejera de medio ambiente no debe ser menos que la consejera de industria en mi punto de vista

al menos igual de firme que lo era cuando usted no era lehendakari porque lo que para el pnv era bueno para los montes de vitoria cuando ustedes no gobernaban

en esta tribuna y también cuando era diputado general era

que los montes de vitoria tengan la mejor figura de protección medioambiental que es la de parque natural no ha cambiado nada bueno sí ha cambiado una cosa

haré referencia en este momento estamos viendo un giro de ciento ochenta grados en la posición del pnv y del gobierno vasco

prácticamente la unanimidad de todos de las asociaciones del ámbito medioambiental y de los ecologistas y el respaldo de la unanimidad del ayuntamiento de vitoria hablamos por tanto

creo recordar del señor maneiro por supuesto grupo popular del grupo socialista que la representación y que hicieron un buen trabajo

del grupo nacionalista pero el gobierno cambia las cosas y no sé qué pasa con esa palabrita en inglés que todo lo cambia

y que hace girar las posiciones de ciento ochenta grados qué tendrá la palabrita en inglés qué tendrá esa palabrita para que el pnv

de los montes de vitoria como parque natural diciendo como se decía que era la figura más adecuada de protección a ahora solamente cubrir poco más

claro curiosamente dejando separado o fuera de esa protección a la zona donde otra consejera área de gobierno quiere aplicar la palabrita en inglés porque no vamos a obviar que detrás del giro de la posición del pnv señor

está el fracking y también pasó con otros gobiernos qué tiene el fracking

la posición de un partido como el suyo qué tiene el fracking para que después de los mandatos del pleno del ayuntamiento de vitoria y de una posición

ampliamente reproducida por los medios de comunicación en voz de responsable máximos del pnv que decían además de fracking ez

también decían para los montes de vitoria queremos lo mejor queremos la máxima protección queremos la protección como parque natural de esas once mil hectáreas que ha cambiado

no consigo explicármelo yo no consigo explicar qué es lo que ha cambiado porque entiendo que legítimamente haya

del gobierno previo puedo entender que su gobierno tenga una posición distinta de la anterior por diferentes razones

y cuando tenía responsabilidades en álava lo que pedía que era lo razonable porque yo estoy de acuerdo con lo que pedía el señor aguirre cuando era diputado general es defender la vitoria que yo desde luego defiendo la vitoria de la green capital no la vitoria de los tubos del fracking que es el paso que vamos a ver

entender una cuestión en primer lugar también lo quiero dejar claro me parece fundamental que se vayan respondiendo de una vez las alegaciones

lo digo porque quien entiende como funcionan los ayuntamientos y los municipios tendrán que recordar que el ayuntamiento de vitoria

y que lo representa su pleno el pleno del ayuntamiento y que las juntas administrativas del sur de la ciudad tienen todo nuestro respeto pero

legítimamente representados por su pleno municipal han establecido unas alegaciones que no coinciden con la propuesta del gobierno vasco ni con la del pnv coinciden con la propuesta unánime que teníamos upyd el grupo popular el grupo socialista entonces en el gobierno y ahora también el

el pnv y esas alegaciones están sin contestar y lo dejan muy claro seguimos pensando lo mismo queremos la vitoria de la green capital esa que decía todos juntos hasta que el pnv rompió la baraja que teníamos que tener los montes de vitoria protegidos con la mejor figura de protección

la figura de parque natural bueno pues esta es la situación que tenemos esa es la situación que hay entonces seguramente podemos hablar de muchísimas cosas técnicas muchísimas y seguramente yo no seré el más indicado para hablar de ellas hay gente que sabe de medioambiente muchísimo más que yo

entre otros luis andrés uribe el técnico del ayuntamiento de vitoria que es

la capital verde europea en el año dos mil doce y que ha trabajado con todos los gobiernos de todos los colores

pero sí tenía la credibilidad técnica del pnv cuando era la oposición y a mí me sorprende

me llena de curiosidad saber qué ha pasado con el pnv en este trámite

y también me pregunto qué hubiese pasado con los montes de vitoria si no hubiesemos tenido rondando como una mosca la palabrita esa en inglés si no estuviese el fracking de por medio

yo estoy convencido de que hubiesemos mantenido los trámites se hubiese terminado los procedimientos y hoy tendríamos declarado parque natural los montes de vitoria y estaríamos todos

en esta voluntad de declaración de los montes de vitoria como parque natural no hay unos por delante de otros

lad sensibilidades políticas distintas en esto vamos juntos

y todos los partidos que tenían representación allí decíamos lo mismo íbamos de la mano de los técnicos íbamos de la mano de los responsables de asociaciones ecológicas íbamos de la mano de todo el mundo para decir juntos green capital

es incompatible con dejar a medias la figura de protección de los montes de vitoria pero insisto yo no sé qué pasa por ahí

no sé qué es lo que pasa y no sé qué explicación técnica puede haber a mí me gustaría que este asunto pudiese ser distinto y que

debe hacer una reflexión porque no estaba solo y las cosas en las que se trabaja de una forma reposada consensuada

una base suficiente como para construir sobre ello tiene un valor muy importante y usted que además creo que en esto coincide como pienso yo que es

en este asunto de los montes de vitoria se había hechoun trabajo extraordinario y seguramente y se lo voy a reconocer

acertadas del entonces diputado general a lo mejor no tendríamos el inicio de ese expediente del prn o de la declaración de parque natural

como diputado general el problema es que ha cambiado ahora su discurso a los miembros del pnv de álava que le llevan la contraria y que insinúan que aquí

hay algo que cambia voluntades me parece que es

ojalá ustedes puedan entender eso y ojalá que en el ámbito del medio ambiente que es una seña de identidad del municipio de vitoria se mantenga la unanimidad que durante décadas desde la época del alcalde josé ángel cuerda se ha mantenido en el ayuntamiento para conseguir

ser un ejemplo en europa en materia medioambiental y ha trabajado duro en esto diferentes gobiernos y todos los representantes

de bildu hasta ustedes aquellos los nuestros todos y también los que no tienen representación en el pleno del ayuntamiento que la han tenido o que no la tienen

es fundamental volver a la senda del sentido común hay una cuestión también importante en la política y ustedes yo creo que la conocen

no son simplemente como se cuentan a veces las cosas son como parece que son y mi impresión lo digo en este sentido si humildemente es que hay un sentir generalizado en la ciudad de vitoria

hay un cambio de posición inexplicable por parte del pnv en relación a los montes de vitoria porque está el fracking de por medio

ese sentir generalizado que hay en muchos ciudadanos de vitoria y seguramente se puede hacer este debate sobre los montes de vitoria sin usar la palabrita en inglés pero en la calle está ahí entonces a mí me parece también importante debate sereno tratar de si eso no es así dejarlo

la mejor fórmula de hacerlo es decir recuperemos la senda del consenso que nos ha llevado a poder decir que respaldábamos a los equipos técnicos nada más y nada menos que consiguieron meter la cabeza del medio ambiente en europa y llevarse un premio que ningún país del sur de europa tiene y que ninguna ciudad de nuestro país tiene que es

por los proyectos que estaban en cartera entre otras cosas también la declaración de parque natural de los montes de vitoria les hago una invitación

en este tema de los montes de vitoria el pnv no puede pasar de encabezar la manifestación a meter la cabeza

si son hábiles y me consta que lo son sáquenla explíquenlo bien hoy hay una oportunidad si

pero desde luego no tienen que convencerme a mí sino a una mayoría importante en la ciudad de vitoria que considera
de este asunto de los montes de vitoria está lo digo la última vez esa palabrita en inglés muchas gracias eskerrik asko maroto jauna

la postura de eaj pnv sobre la extracción de esta reserva energética es clara ni explotación ni exploración hauek izan ziren kanpainan urkulluren

fracking ni exploración ni explotación baina

si no garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental eta azken esaldi honek

sinatu zuelako eta agindu horrek horrela esaten zuen el área de los montes de vitoria se trata de una de las zonas de mayor singularidad e interés ambiental de álava y presenta un gran potencial natural con buen estado de conservación

con varios de los criterios orientativos recogidos en la legislación a este respecto el documento aprobado inicialmente concluye que del estudio y valoración del territorio que abarca el ámbito de los montes de vitoria y estaban hablando de once mil hectáreas no de dos mil hectáreas

espacio en la red de espacios naturales protegidos se estima que la figura de protección que más se adecua al mismo es la del parque natural eusko jaurlaritza

fracking a defendatzeko horregatik

sí gracias presidenta y buenos días a todos como ya se ha dicho aquí esta

una iniciativa similar se debatió hace unos días en las juntas generales de álava y parece que hoy repetiremos el resultado de la votación y aunque

una de las bases de su argumentación que sea esa crítica acérrima

pero que sorprende viniendo del partido popular cuando precisamente la posición de su partido político no es

aunque ojalá a partir de ahora sea así y nos encontremos en el camino en las enmiendas y en el debate de la ilp que está en el parlamento vasco

donde un día exigía parque natural hoy de eso parece que no dice nada importante que esta cámara se pronuncie al respecto para que el gobierno vasco modifique su intención muchas veces declarada aunque es verdad unas veces de una forma y otras veces de otra el departamento liderado por la señora oregi hoy presente en este no tiene ninguna intención de declarar los montes de vitoria parque natural argumentando causas ambientales aunque todos tenemos claro que un tipo de protección más permisiva

que una mayoría política y ciudadana niegan y rechazan de una forma clara y efectivamente sí señor maroto estamos hablando

en el año dos mil nueve el gobierno de patxi lópez es el que comienza el trámite de declaración de los montes de vitoria como parque natural

una preocupación y una conciencia ciudadana y una posición política clara al respecto

plan de ordenación de los recursos naturales buscando la compatibilidad de las actividades agropecuarias y poblacionales con el nivel de protección que requieren los montes de vitoria

esta como muchas de las decisiones que toma este gobierno vasco es totalmente unilateral el ejecutivo comunica en junio del año pasado

y sin tener en cuenta a nadie excepto a los intereses de

objetivos planes o intenciones que nadie se atreve muy bien a explicar y se llegaba a junio después de dos años de marear dos años de dilación en la resolución de las alegaciones retrasando innecesariamente el expediente administrativo de parque natural

el espacio natural que se pretende proteger en una decisión en opinión de los socialistas atropellada desde cualquier punto de vista por un lado se obvian las adversidades ambientales no se prioriza la necesidad de protección

por otro lado ni se escucha ni se atienden las demandas de las entidades locales se mantiene una actitud opaca al respecto de la decisión y lo que es peor se construye un discurso político

es diferente en función de quien gobierna si el gobierno es liderado por el partido nacionalista vasco hay un criterio si el gobierno vasco lo lidera el señor lópez hay otro es decir que si uno gobierna o si está en la oposición la opinión ambiental parece que cambia

ya se aprobó en este parlamento una enmienda por unanimidad en sesión plenaria que pedía que los montes de vitoria fueran parque natural una de las

era la coherencia por la postura política mantenida y votada curiosamente las juntas generales de bizkaia y por otro lado por aspectos naturalísticos en la necesidad de proteger más de trece mil hectáreas

parece que ni coherencia ni aspectos naturalísticos porque se han debido de evaporar y parece que hoy la decisión del pnv es otra pero por seguir con las incoherencias diré en noviembre de dos mil nueve con un alcalde socialista en vitoria el señor lazcoz la oposición digo entrecomillado porque era de forma textual pide que se declare parque natural a los montes de vitoria en esa moción municipal se exigía la actuación del gobierno vasco

el mismo partido votó en contra de una iniciativa para pedir al gobierno vasco que los montes de vitoria fueran declarados parque natural con una justificación cuando menos variopinta autonomía de los municipios esgrimía el partido nacionalista vasco autonomía como siempre donde interesa y cuando interesa y el dos de agosto de dos mil catorce la consejera oregi justifica la posición del gobierno vasco

afirmando digo entrecomillado hay que hacer caso al pueblo increíble

los nacionalistas pedían una máxima protección para los montes de vitoria

de qué persona hable o haga las declaraciones parece que la opinión ambiental es una u otra

lakua el pnv vuelve a pedir esa figura de protección al gobierno en ese momento el problema

pero esa dificultad hoy ya no existe por lo tanto no hay excusa

en la preocupación que antes era enorme del partido nacionalista vasco por la zona y que ahora parece que todo da igual el partido nacionalista vasco plantea declarar los montes de vitoria zona zec y puede que es una figura de protección que todos reconocemos también para otras zonas de la comunidad autónoma vasca pero nos parece que este caso es insuficiente sabemos que quedarían

mientras una protección prohíbe determinados usos la otra simplemente invita a evitar por lo tanto la defensa del medio ambiente su protección y sus valores quedan al albur de las decisiones que el gobierno de turno quiera explotar y llegados a este punto con las posiciones de unos y otros claras o más o menos claras queda un tema por tocar

la desprotección que el pnv nos propone hoy a través de su enmienda posibilita permite y no cuestiona

y aquí tengo que reconocer que el señor maroto a través de su iniciativa se autoexcluye de la toma de decisión respecto a este asunto y hecha los balones fuera

de decir sí o no a la explotación del fracking la necesidad de protección del espacio natural

naturales ambientales y por supuesto políticos por tanto tenemos a un pnv que ha vuelto a cambiar de posición porque ha cambiado de posición ya por segunda vez una el parque natural y otra el tema del fracking el señor urkullu en campaña electoral dice unas cosas y cuando gobierna dice otras

más recientemente se percibe la conservación de la biodiversidad como un concepto fundamental y que nace como respuesta al deterioro progresivo y las amenazas crecientes

inicia el procedimiento mediante la orden de inicio de una tramitación exigida y reclamada y que en aquel momento parece que la queríamos todos pero como en todo hay que intentar sacar una lectura que sirva para algo si debiéramos señalar una enseñanza en esta historia es que la participación pública y la lealtad institucional

para el buen fin de conservación siendo como es una actividad que precisa un diseño para ser eficaz en términos de bienestar ciudadano y no un motivo de enfrentamiento social

y estamos ante una enmienda como ya se ha dicho aquí firmada y que vamos a votar todos los miembros de esta cámara excepto el partido nacionalista vasco pues ya me explicarán cómo van a explicarle

el cambio de posición ya me explicarán cómo van a decir que siguen diciendo al fracking sí pero no

cuando al final va a caer la selecciones y las enmiendas del partido nacionalista vasco van a tener que estar sobre la mesa por lo tanto creo que vuelven a tener un problema y vuelven a no decir nada al respecto solo espero una cosa

de todos excepto el grupo que sustenta al gobierno por favor cumplan el mandato parlamentario y hagan

parque natural lo han pedido las juntas lo ha pedido el ayuntamiento lo ha pedido el parlamento no una vez

y así es como lo reclaman los colectivos ecologistas por lo tanto creo que ya llega el momento de hablar claro creo que llega el momento de que quizás en campaña electoral se les pregunte y efectivamente se pronuncien sobre los temas también medioambientales y de que por fin digan qué es lo que opinan sobre la posibilidad de desarrollar el fracking sí o no en los montes de vitoria

porque es lo que reclama la mayoría social aquí representada y se han quedado solos

venían defendiendo hasta hace dos días nada más muchas gracias eskerrik asko

por si no supiéramos que estamos en campaña electoral esta iniciativa nos lo viene a recordar

es una iniciativa presentada en el pasado mes de junio que se activa ahora nueve meses después para que coincida con la

sino del fracking un debate que efectivamente se producirá en

y en el que veremos la postura de cada uno y particularmente la de uno de los proponentes la postura del partido popular la postura de nuestro grupo en esta materia a pesar

la misma en la pasada legislatura como en esta es que se está tramitando el

en el año dos mil cuatro el área geográfica conocida como montes de vitoria por cierto además de vitoria

decía que los montes de vitoria se incluyeron por decisión de la comisión europea

para la conformación de la red ecológica europea red natura dos mil los montes de vitoria por tanto forman parte de una red de la máxima protección a nivel europeo en el año dos mil diez el gobierno vasco adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de elaboración del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales como ya se ha indicado

en aquella época y esto va dirigido para algunos que

incluidos en la citada red natura dos mil posteriormente en el año dos mil once se modificó la citada ley y se incluyeron en la misma las figuras de protección a la que me refiero en estos momentos que no existían en el año dos mil once y en la que se ha referido el señor maroto

una ley por cierto en la que alguno de los grupos que proponen en concreto la moción

nos pusieron a caldo de perejil no participaron en su elaboración y ahora parece que es el bálsamo de para resolver el problema del fracking eso se llama coherencia

debe ser la consecuencia de las propuestas técnicas de protección de este espacio

recibidas cuarenta y tres pedían desistir de esta iniciativa y también es importante

sobre este punto debemos decir que de los siete municipios afectados seis se han pronunciado

y entendemos que la elección de la figura más adecuada le corresponde al gobierno previo análisis ponderado de los hechos e intereses que pivotan en torno a esta decisión

y este consejo ya adoptó en el mes de diciembre pasado el acuerdo de informar favorablemente la propuesta al departamento de declarar

que es una de las figuras previstas en la ley para la protección de la red natura dos mil

al dieciocho y pico por ciento del territorio europeo de una red que por cierto se está protegiendo con bastante retraso y que según hemos tenido noticias

la comisión europea ha emitido una carta de emplazamiento por infracción al reino de españa que afectaría sin duda a los montes de vitoria conviene recordar que este parlamento ya ha mandatado al gobierno sobre la forma de actuar en esta materia porque las leyes son mandatos del parlamento al gobierno

el gobierno insisto por mandato de este parlamento puede elegir cualquiera de las cinco figuras previstas en la ley

no es que nos movamos en la línea separadora entre lo que es una función legislativa y una función ejecutiva sino que claramente

con la propuesta que ahora debatimos se pretende que este parlamento en contra de un mandato legal anterior

se está produciendo una invasión competencial del legislativo en el ejecutivo si este parlamento quiere decidir sobre la protección de los montes de vitoria lo que tiene que hacer es cambiar la ley y atribuirse esa competencia este parlamento le tiene que pedir al gobierno que actúe conforme a la ley en este caso son básicamente

de euskadi y sobre esto debemos decir que el gobierno vasco está actuando de acuerdo con la ley en el proceso de decisión para la protección de los montes de vitoria lo que aquí se ha traído

sino su utilización espúrea para otros fines por hablar por ejemplo no se habla hoy pero otras veces sí de la cárcel de zaballa o del fracking largo y tendido en esta misma mañana un debate

próximamente en esta cámara por cierto muchas personas desconocen que en el interior de la propuesta del parque natural de vitoria se haya el mayor vertedero de álava

una protección superior a la que a través de esta propuesta se exige al gobierno señor maroto o la diputación foral de álava puede establecer también una protección superior a través del

es decir desde el ayuntamiento de vitoria y de juntas generales se piden a los demás al gobierno que hagan lo que uno no quiere hacer señor maroto

modifique el plan general e introduzca esta prohibición seguramente no se atreverá por eso el punto segundo de nuestra enmienda dice que instamos a la diputación foral de álava y al ayuntamiento concernidos a desarrollar y a aplicar en el ejercicio de sus competencias de

para la protección de los valores naturales del área montes de vitoria algunos otros no se sabe si suben o si bajan si van o vienen

si proteger este espacio como parque natural o bien a través de otra figura y me refiero con esto

en su parte expositiva le recuerdo decía literalmente previa su declaración como

a la naturaleza del espacio y esto es justamente señora rojo lo que nosotros hemos planteado en nuestra enmienda que se ajuste

a lo que resulte del plan de ordenación de los recursos naturales también la pasado legislatura

del anterior gobierno socialista dijo públicamente que en el área de los montes de vitoria no existen valores naturales que deban ser protegidos mediante la figura del parque natural literalmente dijo que los montes de vitoria no son el serengeti señora rojo como conclusión de todo ello

creemos que existe un consenso absoluto en la necesidad de establecer un sistema de protección de los valores naturalísticos de los montes de vitoria no obstante diferimos en cuál debe ser la herramienta la figura más adecuada para conseguir estos objetivos señora rojo

no proponemos una figura concreta sino que lo que hacemos es remitir a lo que resulte de los acuerdos entre administraciones y de las alegaciones producidas en el periodo de elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales nosotros entendemos que debe serlo

mediante algunas de las figuras de la red natura dos mil con el contenido de lo señalado en la ley de conservación de la naturaleza y ustedes pretenden que se declare parque natural

de referirse a parque natural se refiriese por ejemplo

el gobierno al promover la protección de los montes de vitoria bajo la figura

y por cierto señor maeztu el tratamiento del fracking tanto

es el mismo en ambos caso por lo tanto no hay ninguna diferencia no debiera haber al respecto

los usos permitidos y prohibidos por tanto no se trata de calidad de figura elegida

bastante sencillas yo diría que son bastante de la calle a ver si consigo

voy a utilizar el argumentario de la señora rojo porque me ha parecido que lo tenía muy bien

de lo que el pnv hace con los montes de vitoria si ha pasado esto uno

eran los que pedían en el pleno del ayuntamiento de vitoria que se eligiese la figura de protección de máximo rigor

de parque natural para los montes de vitoria eso hacía el pnv cuando estaba en la oposición del señor lazcoz

estaba de diputado general decía lo mismo lo pedía

lo digo en positivo cuando

es lehendakari los del pnv

con lo que le habían dicho que había que hacer y entonces seguía diciendo no al fracking los montes de vitoria

le dice a callar que no que hemos cambiado

a callar y entonces ahora lo que sucede efectivamente es que el pnv también en vitoria que no tiene ninguna autonomía para tomar decisiones propias lo que hace es votar en contra de lo que quiere la mayoría de vitoria y a favor de dejar la puerta abierta al fracking entonces primera pregunta

qué quieren que piense con todo ese giro pues yo lo que pensaría es además de que el grupo municipal en el ayuntamiento no tiene autonomía esa cuestión para mi no es nueva pero en todo caso lo que si la gente es oiga los del pnv

los que decían que estaban con lo de green capital y a la primera de cambio y no se por qué razones a lo mejor alguna consejera lo sabe yo no estoy en esos despachos por no se qué razones ahora el pnv dice a los de vitoria a callar

y no solo callan si no que además votan en contra de lo que decían

y ahora el pnv de vitoria lo que hace es decir a los montes de vitoria si te he visto no me acuerdo

y dejamos abierta la puerta al fracking eso es gravísimo en un partido como el suyo es gravísimo y la segunda pregunta esta es para el señor urkullu aunque ya se que no me toca ya sé que el procedimiento aquí es distinto y que no puedo hablar con él pero lo dejo por si lo puede oír la segunda de las preguntas es la clave oiga para lo que quiere el pnv cuando le gusta lo que sale en este parlamento

dicen lo ha aprobado el parlamento lo voy a hacer

hoy el parlamento vasco por una amplísima mayoría va a decir que quiere para los montes de vitoria la máxima figura de protección que es la de parque natural señor

o no este mandato del pleno del parlamento del día de hoy ya sé que es excederme en el reglamento pedir un gesto con la cabeza

pero en ausencia de gestos y en ausencia de palabras hay un refrán castellano que dice que el que calla otorga y me temo que su respuesta es lo siento pero no ahí os quedáis con los montes de vitoria como queremos ahora

y eso fíjese usted lo que ha conseguido nos une a nosotros con esos señores con aquellos de allí y con el señor que se sienta ahí arriba que casi nunca estamos de acuerdo

yo haría esa reflexión desde luego los vitorianos se la están haciendo a mí me lo preguntan

qué ha pasado en el pnv qué ha pasado con el grupo municipal qué ha pasado con el anterior diputado general

parlamentario del pnv qué ha pasado con el lehendakari qué pasa en el país vasco con el fracking pero que tiene el fracking qué tiene

que hay detrás qué es lo que hay para que un asunto tan importante tan verde

tan sostenible tan unánime como era la protección del parque natural se quiebre por decisión unilateral qué hay ahí qué hay detrás

elecciones municipales del ayuntamiento de gasteiz diciendo que los montes de vitoria debían ser parque natural y viene así recogido no decía nada de la red natura dos mil ni de ser

y por lo tanto tienen que coger argumentaciones que o no tienen ninguna base o simplemente son falsas es falso que seis de siete ayuntamientos se hayan opuesto a la declaración del parque natural solo hay que leerse las alegaciones

este ayuntamiento considera que las entidades afectadas como en este caso el concejo de oquina debía haber participado en los tramites de consulta informaciones previas y de limitación del ámbito ausencia que ha derivado en la oposición de esta entidad a la inclusión de los terrenos dentro del ámbito del plan no se opone al parque natural se opone a como se ha gestionado el plan de ordenación de recursos naturales sin tenerles en cuenta pero sigo leyendo

de hecho es imprescindible para el funcionamiento del parque y la consecución de los objetivos previstos que la población rural de los núcleos afectados de la declaración y el propio sector agroganadero se sientan integrados y comprometidos en el proyecto sin ver menoscabadas sus opciones personales o sectoriales no se oponen al plan piden que se les tenga en cuenta

tras estas observaciones quisiéramos indicar que ni la junta administrativa de eguileta

aunque sí consideramos necesario que se revisen los puntos aquí expuestos antes de creación definitiva y podría seguir leyendo lo que dice el ayuntamiento

se oponen a que no se les haya tenido en cuenta a la hora de hacer el plan de ordenación de los recursos naturales que es diferente porque por desgracia en este país muchas veces se han hecho también parques naturales sin contar con los pueblos ni con el desarrollo socio económico de los pueblos que están dentro de ese parque natural lo cual no quiere decir

de parque natural y el debate no es el que usted quiere si lo que dice la legislación cuál es la calidad o el contenido de la figura

es mucho mas sencillo y lo voy a hacer siguiendo a un programa

simplemente grande el ámbito de una gran protección pequeño el ámbito que ustedes quieren proteger

hay dos pozos enara uno y dos de fracking propiedad de shesa empresa cien por ciento del gobierno vasco

no se protegen quedan fuera de esa protección

este es el debate y esta es la cuestión que ustedes intentan esconder le he hecho también una serie de preguntas si tienen en su poder informes técnicos que contradigan los informes que en su día el año dos mil diez se hicieron para firmar una orden que ponía en marcha el plan de ordenación de los recursos naturales del parque natural de los montes de gasteiz se lo pido pero que diga en qué se equivocaban aquellos informes técnicos que decían que la mejor forma de proteger